gracias señora presidenta buenas tardes a todos como hemos adelantado en el debate previo nuestras propuestas de resolución van destinadas a completar

que nos ha traído el gobierno no vamos a detalles de actuaciones porque no creemos que correspondan a este debate tan general acerca de la planificación sanitaria

o los grupos parlamentarios para la consecución de estos objetivos marcados aunque sí consideramos que hay que presentar

y reforzar algún compromiso el primero de ellos la suficiencia presupuestaria

hay que dotarlo de los recursos necesarios no significa que haya que plantear extravagancias financieras decidimos qué queremos primero y después cómo pagarlo es decir vamos a señalar en cada año antes

lo venimos haciendo desde hace años pero en especial desde que ha estallado la actual crisis por ello y porque el plan compromete al actual gobierno y al que le siga queremos

la suficiencia presupuestaria que haga posible perseverar en el sistema público de salud las características de universal equitativo y de calidad con las adaptaciones que la situación económica y social de forma que ningún ciudadano residente en euskadi vea restringido su derecho a la salud en ninguna de las fases preventivas asistenciales y rehabilitadoras

pedimos que esas recomendaciones se presenten en comisión

el trámite presupuestario proponemos también la participación de las organizaciones sociales conocedoras de las realidades que viven familias y particulares

que se contemplan ya en este plan completamos las actuaciones sociales que inciden en la salud siguiendo los objetivos del plan en materia de vivienda pobreza energética detección de malnutrición entre los escolares también tenemos todavía pendientes

o una proposición no de ley para actuar en los colegios pero consideramos que deben de formar parte de la estrategia de salud

incorporamos también en estas proposiciones al plan de salud

ya aprobados que también deben de ser entendidos como estratégicos tal y como es la transparencia en la gestión de las listas de espera

en este caso reconoce la importancia de la lactancia materna nada más coherente por lo tanto que dar el paso siguiente que es facilitar la lactancia materna

sean niños de bajo peso sean niños prematuros o muy prematuros

bien sea de su propia madre o bien sea a través de un banco de leche materna también buscamos compromisos de actuación para esta legislatura

en dos mil dieciséis la carta de derechos y deberes de pacientes creación de la unidad administrativa coordinadora de políticas de igualdad creación del observatorio vasco de la salud inclusión de las variables de estratificación social en los sistemas de información sanitaria

plan de formación de personas cuidadoras prescripción compartida programa de vigilancia antimicrobiana y resistencias entre otras también

inicialmente proponíamos en tres meses hemos transado alargar los plazos para que el gobierno tenga más posibilidades de cumplir exactamente estos compromisos la formación de profesionales en las áreas que el plan considera necesarias para que esa formación

deje de tener la tutela económica que podría tenerlo y que significaría la sospecha de una interrelación no correcta no adecuada que no cumple el plan ético de este gobierno entre la industria farmacéutica y los profesionales que prescriben medicamentos

del cien por ciento de la población que lo requiera otra cosa es que se pueda cumplir o no pero la ambición tiene que ser cumplir el cien por ciento para

pacientes oncológicos y la rehabilitación que cómo no nos damos cuenta de la dificultad que significa porque requiere inversiones requiere programa requiere compromisos requiere recursos pero como hemos mencionado a la mañana tiene ahorros a medio y no digamos a largo plazo tanto en el departamento de salud

en el área de servicios sociales así mismo desde el ámbito de la prevención es conveniente que este mismo año

con el grupo que entre comilla soporta al gobierno

al gobierno que cuenten con guías practicas como décimos sobre dolor crónico

en la oferta de asesoramiento genético para pacientes de estas enfermedades raras y sus familiares así como también en prevención

estas son las demandas que nos han traslado las correspondientes asociaciones de afectados nos parece

sería que el departamento contará con la colaboración de las mismas aquí también hay que decir que en este sentido hemos acordado una participación de las organizaciones sociales que tienen palabra conocen muy bien las necesidades y que el departamento va a tener de esta manera un cauce

con su opinión nuestras propuestas se completan con la apuesta por la investigación biomédica pedimos que en seis meses se evalúe se valore

para establecer estrategias de apoyo a la investigación biomédica y socio sanitaria así como su aplicación en la practica sanitaria diaria

de resolución vamos a contribuir a mejorar el plan en cuanto a su filosofía buscando la suficiencia presupuestaria

proponiendo objetivos que actualmente no presenta el plan objetivos de cobertura de la población no basados en objetivos médicos en indicadores médicos sino en actuaciones revisiones de pacientes con cáncer rehabilitación algunas carencias que tenía el plan para

las desigualdades a las que se refiere el propio plan y que nuestras

incorporan como décimos objetivos concretos además de haber transado con el grupo nacionalistas vascos hemos

no solo en la apreciación a la mañana respecto a la valoración del plan sino en las medidas que en todo caso podrían considerarse prácticamente de adición la mayoría de ellas y que en algún caso nuestro grupo ha decidido abstenerse o votar en contra en algunas de ellas no es tanto por no coincidir con el contenido sino porque creemos que no es el momento del debate a la hora de hablar de un plan creemos que no se debe de extender tanto

más propias de debates parlamentarios posteriores y que evidentemente en su momento naturalmente no tendremos ningún problema en acordar pero como digo en este momento hemos decidido

a algunas iniciativas de otros grupos que por otro lado nos parecen sumamente interesantes pero como décimos para un debate posterior y nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal

sí gracias presidenta de manera bastante breve para decir que hemos presentado diez propuestas de resolución con un afán y con una idea

básicamente compartimos los planteamientos y los objetivos del plan de salud dos mil trece dos mil veinte porque plantea como objetivos la universalidad

y la calidad de nuestro sistema sanitario y de las políticas públicas que tienen incidencia en la salud un derecho humano que a toda costa debemos preservar se trata ahora de hacer posible el cumplimiento de estos objetivos y de incorporar algunas reivindicaciones concretas el resto de grupos también ha planteado cuestiones bastante concretas en general las propuestas de resolución que planteamos nosotros

algunos aspectos puntuales en concreto la propuesta de resolución número uno pretende instar al gobierno a no reducir en ningún caso las asignaciones presupuestarias destinadas anualmente al departamento de salud ni aplicar ningún recorte en materia sanitaria de tal forma que puedan desarrollarse con éxito las previsiones incluidas por lo tanto compromiso presupuestario en salud y en todas las políticas que tienen incidencia en la salud oposición por lo tanto a los recortes y a los ajustes a los recortes y a los ajustes impulsados por parte del gobierno de españa y a los recortes y ajustes impulsados también por el gobierno vasco oposición

en este ámbito en el futuro la propuesta de resolución número dos insta al gobierno a introducir una nueva área prioritaria sobre salud y medio ambiente en la que se pudieran identificar los riesgos medioambientales para la salud y sus acciones para minimizarlos así como los indicadores a conseguir en el espacio temporal del plan se trataría de identificar los factores de riesgo ambiental que ocasionan

en cáncer enfermedades respiratorias y alteraciones endocrinas y en el desarrollo neurológico de analizar los factores de riesgo y de proponer

el conjunto de medidas más adecuado para minimizar su impacto en el espacio temporal del plan de salud algo en relación a la cuestión se recoge en el plan pero lo cierto es que sin ningún tipo de profundidad ni medidas ni acciones concretas ni tampoco

a llevar a cabo con la propuesta de resolución número tres proponemos instar al departamento a definir un plan específico

un modelo asistencial específico para la organización del diagnóstico y el tratamiento del cáncer en la línea con las propuestas que se realizan en la mayoría de los países de nuestro entorno y siguiendo por cierto las recomendaciones de la estrategia en cáncer del sistema nacional de salud unión europea con la propuesta de resolución número cuatro lo que proponemos es instar al gobierno a aumentar y sistematizar la coordinación con los servicios sociales y la red socio sanitaria para mejorar la eficacia y la eficiencia del plan de salud

y la cronicidad en este sentido proponemos que este parlamento ratifique su propuesta de introducir en la red de centros sanitarios especialistas en geriatría con la propuesta de resolución número cinco proponemos instar al gobierno a introducir dentro del plan como un objetivo específico

y los objetivos a conseguir en los próximos años cosa que en el plan del gobierno

con la propuesta de resolución número seis proponemos instar al gobierno a introducir dentro del plan como un objetivo específico la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica detallando las actuaciones concretas para hacer frente a ellas y los objetivos a conseguir en los próximos años

no realiza y con la propuesta de resolución número siete proponemos instar al gobierno a introducir dentro de este plan

en los próximos años con la propuesta de resolución número ocho instamos al gobierno a informar de forma periódica de las evaluaciones de los resultados del plan de salud proponemos que se remita el informe anual

todas las políticas y las evaluaciones del comité técnico del plan de salud instamos a que el propio consejero

anualmente para informar del desarrollo evolución y grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de salud con la propuesta de resolución número nueve proponemos instar al gobierno a reforzar el área de investigación dentro de los objetivos del plan de salud introduciendo nuevos indicadores y objetivos a conseguir dentro de su espacio temporal instamos a acelerar la constitución

en álava dentro de la estructura del hospital universitario de álava y finalmente instamos al gobierno a concretar el objetivo de reducción de pacientes en las listas de espera

especializadas en este punto reitero lo señalado por la mañana está pendiente de

verdaderamente transparente tanto en lo que se refiere a la información que se traslada a los ciudadanos como en la propia elaboración de las listas de espera

respecto al resto de las propuestas de resolución votaríamos en principio a favor de todas las propuestas de resolución del grupo socialista

a favor de la mayoría de las propuestas de resolución del partido popular y en relación a las propuestas del partido nacionalista vasco puesto que han sido retiradas la mayoría de ellas

a la propuesta número cinco y votaríamos a favor también de las transaccionales firmadas entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialistas

con nuestras propuestas con nuestro discurso con nuestro voto una sanidad pública una sanidad de calidad una sanidad equitativa y una sanidad universal amenazada todo hay que decirlo porque está amenazada hoy por quienes quieren privatizarlo todo e impulsar nuevos

observamos que algunas de las propuestas de resolución planteadas por los distintos grupos digamos que amplían el debate y la temática

pobreza energética lactancia materna y un larguísimo etcétera

muchas de las propuestas que se plantean por los diferentes grupos son propuestas muy interesantes votaríamos a favor por lo tanto de esas propuestas de resolución

señorías lehendakari señor consejero buenas tardes mi grupo ha presentado cincuenta propuestas de resolución que corresponden a veintidós ejes o veintidós apartados u objetivos contenidos en el plan debatido esta mañana

de nueva creación pero en cualquier caso perfectamente integrados en el debate de la mañana bien este es el momento de ser exigente

es un plan para siete años hoy es el punto de partida parlamentario por eso esta cámara adopta también no solamente el gobierno también esta cámara una responsabilidad ya que si ahora

durante los próximos siete años hay que ir controlando hay que ir supervisando todas esas propuestas todas esas actuaciones de los que hoy se pone el fundamento está claro que este plan será una actuación continuada en el tiempo y que se irá amoldando a necesidades y continuados la señora garrido en su intervención de esta mañana ya ha marcado perfectamente las líneas de análisis del plan de salud y nuestra posición

en lo que debe de ser su desarrollo y su acomodo permanentes a las necesidades de salud por ello las siguientes propuestas de resolución buscan aportar elementos necesarios a las políticas de salud para esos próximos años

dos legislaturas prácticamente este y la siguiente un tiempo importante

lo es en relación con nuestra posición en la construcción de las propuestas de resolución los contactos previos a la presentación de estas propuestas de resolución

las propuestas después de estas negociaciones de esos contactos de esos debates y así poder evitar también una colección

o despistan pero en cualquier caso esos contactos previos que la señora garrido ha mantenido con los portavoces

las propuestas de resolución que presentamos a la consideración de la cámara en relación con las mismas

la mención a los compromisos recogidos en el libro blanco sobre la nueva gobernanza en europa en el apartado eje conductor del plan

en el libro blanco sobre la nueva gobernanza en europa cuestiones siempre fundamentales en lo que es la coordinación y el marco en el que nos movemos también en lo que es de referencia a las orientaciones de países y organismos expertos dos mil trece

décimos que se incluya dentro del plan de salud la referencia al plan de calidad dos mil diez del sistema nacional de salud también décimos como elemento fundamental porque hablamos de

como órgano permanente de coordinación cooperación comunicación información de los servicios de salud entre ellos con la administración general del estado está bien claro que estamos permanentemente interrelacionados en estas cuestiones lo vemos todos los días y en este sentido es bueno que se ponga de manifiesto también las claves de la eficacia la eficiencia y la calidad de las políticas de salud radica en la coordinación en la colaboración efectiva con las instituciones competentes en materia de salud en el ámbito estatal en el ámbito europeo en el ámbito de las comunidades autónomas sobre todo de las vecinas

en relación con el objetivo de la equidad también tenemos tres propuestas de resolución una de ellas

circunstancias personales sociales o culturales se encuentran en situación de especial

o menores jóvenes es decir es una cuestión importante también

en el ámbito rural especialmente el de las personas mayores con objeto de seguir avanzando en las dificultades que puedan tener en la accesibilidad a los diferentes servicios asistenciales y también adoptar medidas especificas dirigidas a los colectivos más vulnerables como personas con sensibilidad especial a determinados contaminantes niños ancianos y personas con una predisposición especial en relación con el objetivo de la participación y

presentamos cinco propuestas de resolución resumidas y dirigidas a concienciar a los pacientes de su enfermedad

en su propio tratamiento y la responsabilidad en los cuidados de salud también a reforzar el autocuidado mediante la promoción de la salud y programas específicos de educación para la salud otra sería seguir desarrollando e implantando sistemas de contacto multicanal aprovechando las nuevas tecnologías

también a impulsar nuevos mecanismos de participación con las asociaciones de enfermos familiares y cuidadores con el fin de recavar su opinión y de ser proactivos también

de la salud con todos estos colectivos también como otra propuesta de resolución el hecho de adoptar medidas encaminadas a la despolitización de los gestores de los niveles del ámbito sanitario y aún mayor amparo de las decisiones médicas

otras cinco propuestas de resolución van en el sentido siguiente

la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo de los proyectos de investigación en los ámbitos de actuación definidos en el plan de salud de euskadi dos mil trece dos mil veinte

que siempre es bueno destacarlo hay que tenerlo como referencia y así lo hacemos en esta propuesta

y en la mejora del sistema cómo no reforzar los sistemas orientados hacía la excelencia e incorporar la cultura de la innovación en los distintos ámbitos de actividad

también a impulsar acciones en materia de genética en relación con estas cuestiones

colaboración con la comunidad científica y la iniciativa privada para el desarrollo de programas múltiples de investigación en relación con

uso adecuado de fármacos también presentamos cinco propuestas de resolución encaminadas

a la historia clínica del paciente por parte de los agentes sanitarios con objeto de mejorar la adherencia al tratamiento y el buen uso de los medicamentos así como evitar su interacción y su solapamiento

para su implantación en las oficinas de farmacia también hablamos y pedimos ampliar el programa del sistema personalizado de dosificación a otros colectivos especialmente a personas en el ámbito residencial también poner en marcha un programa que facilite la entrega del test de detección precoz del cáncer de colon al paciente y su devolución

siempre se habla de esta cuestión siempre hay que seguir recordándola y siempre hay que seguir profundizando y supongo que en estos siete años

en relación con el objetivo seguridad clínica presentamos dos propuestas de resolución

a sus necesidades y mejorar también los mecanismos de protección de la confidencialidad en la historia clínica digital de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica de protección de datos y en el reglamento que la

las siguientes acciones dos propuestas de resolución ampliar de forma progresiva el programa de detección precoz del cáncer de mama hasta los cuarenta y cinco años y por otro lado reforzar la atención y proporcionar un tratamiento multidisciplinario y preferente

las técnicas más avanzadas y en lo relativo a las enfermedades cardiovasculares otras dos propuestas de resolución en relación con el desarrollo de programas de prevención cardiovascular multidisciplinar y también con

implantando implantar programas de seguimiento de la rehabilitación cardiovascular al inicio de la fase tres de mantenimiento relación con el objetivo dos punto ocho obesidad entendemos que se debe instar al departamento de salud a diseñar programas para

la infantil y también hacerlo en el ámbito educativo en el ámbito de los medios de comunicación en relación con

dos propuestas de resolución encaminadas a lo siguiente la primera protocolizar medidas para la prevención

teniendo en cuenta la perspectiva de género y también a incorporar la atención de trastornos mentales severos con especial énfasis

de coordinación sanitaria y comunitaria en relación con el programa objetivo de infecciones de transmisión sexual una

y embarazos no deseados también en el objetivo otras enfermedades relevantes cuatro propuestas de resolución en relación

también desarrollar propuestas de carácter integral que den respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades raras y también a sus familias elaborar

y tratamiento así como medidas rehabilitadoras y en ese sentido y en esa clave de esas enfermedades elaborar y actualizar los protocolos de atención a la fibromialgia algunos

prácticas para la difusión entre el personal sanitario el objetivo envejecimiento activo la siguiente acción en una propuesta de resolución fomentar la

lo que es la actuación pública y el deseo de que así sea pero fomentar la participación activa del paciente mayor dependiente y de su familia de manera que se convierta

de superar en el ámbito de la salud los problemas que le causa esa enfermedad por otro lado

seis propuestas de resolución mejorar el modelo de estratificación de la población en función de las necesidades asistenciales y del consumo de recursos permitiendo el diseño de acciones especificas de cada grupo con especial énfasis en los pluripatologicos

reforzar todas aquellas medidas que garanticen la continuidad de cuidados asistenciales a los enfermos crónicos

y servicios que interactúan también reforzar las medidas para realizar un correcto seguimiento de los enfermos crónicos con el diseño de programas de formación específicos y dirigidos a la implicación del paciente

esto tiene que ser una constante y también a involucrar de manera más efectiva al conjunto del personal sanitario en la

crónicos desarrollando actuaciones en el ámbito formativo y también una cuestión fundamental clásica ya en las reivindicaciones de este parlamento

reivindicación histórica de la que hemos debatido muchas veces a lo largo de muchas legislaturas pero que todavía es una asignatura pendiente

una acción una propuesta de resolución difundir los beneficios del agua como elemento hidratador primordial en las dietas de las personas en relación con el objetivo salud sexual y reproductiva desarrollar esos programas de información de asesoramiento hacerlo en mayor medida sobre la utilización de métodos anticonceptivos

información sobre los riesgos de la anticoncepción de emergencia en relación con el objetivo
adiciones consideramos necesario establecer una relación isiltasuna mesedez isiltasuna

una relación fluida coordinada en claves de salud y asistencia sanitaria con las previsiones contenidas en el plan nacional de drogas

es una cuestión importante a la que nosotros damos mucho valor el plan de salud dos mil trece dos mil veinte denomina entorno

debiera de ser salud y medio ambiente o salud y seguridad laboral emplean la expresión entorno no estamos muy de acuerdo es decir

hubiesemos entendido que por claridad y sobre todo porque está bien claro que la salud y el medioambiente están perfectamente identificados y la salud y lo laboral en relación con lo que es la seguridad la salud laboral es también pues adoptan

no es una cuestión excesivamente importante pero nos hubiese gustado la otra denominación

en relación con la evaluación del plan de salud una propuesta de resolución en relación con realizar un informe anual remitirlo al parlamento en relación al cumplimiento de los objetivos y acciones previstas en el plan de salud dos mil trece

como última propuesta de resolución en relación a la financiación instar al departamento de salud a establecer las consignaciones económicas para la consecución de los objetivos previstos también de esto se han hecho eco algunas otras de sus señorías en relación con el resto de grupos apoyaremos buena parte de las propuestas de resolución de otros grupos a nosotros no nos ha importado tanto bajar

estratégicas o líneas de carácter general es un plan para dos legislaturas es un plan para siete años y desde luego en mi grupo ha entendido que es bueno fijar

de una manera concreta y eso hemos tratado de hacer muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andrea zurea da hitza

adostu hablaba usted señora roncal estamos totalmente de acuerdo con usted

generalista de planificación sanitaria como el que hoy nos ocupa en ese sentido habrá algunas propuestas que han presentado los distintos grupos que efectivamente consideramos que no son objeto de debate hoy pero sí que a lo largo de los años cuando el consejero venga

presentar el informe del plan pues sí que serán objeto algunas de ellas de poder abordar concretamente

presupuestaria que tiene que tener y desde luego nosotros apoyamos el compromiso del gobierno en mantener la suficiencia presupuestaria para dotar de recursos las políticas y acciones que se prevén

de lo que usted misma estaba planteando en el inicio de su debate

sí que nos parece importante decir que también con usted hemos llegado a un alto acuerdo porque de las dieciséis

tres las vamos a apoyar y siete hemos conseguido transar del resto por ejemplo podríamos decirle que en el tema de la accesibilidad de listas de espera por decir dos

acordado decirle que aunque estamos a favor de la idea y va en la línea de lo que establece la directiva europea no hemos llegado

por el tipo de acceso que tendrían los pacientes en la espera otro tema concreto también que hemos intentado llegar a un acuerdo pero no ha sido posible

el dolor crónico que usted ha mencionado enfermedades raras y salud mental porque son materias muy extensas materias muy complejas y usted en algunos casos está poniendo al gobierno

del gobierno y nosotros como grupo que les apoyamos es no comprometernos a hacer nada que no estemos más bien

de que vamos a poder cumplir no queremos apoyar iniciativas que luego puedan quedar en el camino hemos estado debatiendo esto y esas han sido las razones

a informar de forma periódica de las evaluaciones de los resultados del plan de salud hau

isiltasuna mesedez aurrerantza egiteko usted decía señor maneiro que comparte la filosofía

los objetivos del plan y nos quedamos con eso también usted nos da su apoyo a pesar que en esas nueve iniciativas

que no llegamos a transar que no llegamos a un acuerdo

ya habrá tiempo para ir avanzando usted apoya el plan que presenta el gobierno pretenden mejorar algunos aspectos decía y como decía uniendo con lo que decía la señora roncal van muy al detalle y son propuestas muy concretas que pueden ser objeto de otras iniciativas pero el plan es mucho más que eso es un instrumento de planificación

y sus iniciativas serán también analizadas y abordadas señor maneiro en una cosa sí estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho y es que ciertamente

el debate se ha abierto hasta lo inesperado se han tocado tantos temas es posible abordar tantas cuestiones que realmente

más complejo la posibilidad de ir negociando

en el que se debate el plan de salud y en ningún caso puede convertirse en un debate de política general donde se aborden todas las cuestiones de distintos departamentos desde

hasta las políticas sociales desde distintos aspectos que hemos estado abordando la política de vivienda cuando estamos

ahora justo en el parlamento se está analizando una proposición de ley de vivienda todo eso no podemos poner deberes a todos los departamentos incluso vulnerando muchas veces

excede de lo que es el ámbito que debe abordar el plan de salud bilduri zuek hogeita hamar

legislaturas decía usted señor barrio y efectivamente

este tiempo se irán concretando y se irán amoldando el plan en cada momento

hemos admitido muchas de las propuestas que ustedes planteaban incorporando pequeños matices que hemos tenido posibilidad de negociar con ustedes y con carácter previo

son iniciativas que ya se están haciendo por tanto

nosotras interpretamos es que están absolutamente alineados con el plan de salud que el consejero

de días como el de hoy parece que los grupos parlamentarios y también el propio consejero

porque nos preocupan los mismos temas compartimos también ámbitos de intervención todo eso lo hemos visto durante la mañana

de mostrar de tomar decisiones y de mostrar el grado del compromiso de cada uno ahora es cuando verdaderamente tenemos la oportunidad de ver por donde vamos cada grupo parlamentario y ahí se demuestra las desigualdades no las desigualdades del plan de salud de las que hemos estado hablando

sino las desigualdades del grado de compromiso de cada grupo parlamentario nosotras no hemos bajado tanto en las propuestas de resolución a las concreciones ni a la asistencia porque creemos que eso se tenía que recoger en un plan

cuestión nuestra no sé si se ha llegado a entender el enfoque que le queríamos dar a nuestras propuestas de resolución

interinstitucional interdepartamental y con eso estábamos completamente de acuerdo lo hemos dicho esta mañana

lo compartíamos por eso nuestras propuestas de resolución han ido encaminadas en ese sentido y no nos duele en prenda a instar a otros departamentos

la comisión directora del plan de salud donde hemos pedido que esté emakunde también están todas las viceconsejerias estas viceconsejerias dicen que

aquí también se tiene que hablar de vivienda aquí también se tiene que hablar de política sociales porque cuando hablamos de personas que no tiene vivienda y que viven en la calle

tienen una relación directa con la buena o mala salud que tengan o con la mejor o peor salud que tengan por eso es por lo que instábamos a las políticas de vivienda una cosa a las de educación a otra las de políticas sociales

en las cuestiones de salud nos hemos circunscrito

a los ejes a los objetivos a las aportaciones que establecía y que describía el propio plan y con el fin con el fin de subrayar

hemos incluido precisamente hemos subrayado algunas de ellas poniendo también acentos diciendo que se desarrollen que se refuercen que se amplíen que se potencien o que se pongan en marcha es decir hemos hecho un trabajo de entendiendo lo que el plan contenía también reforzarlo con unos criterios que puedan entrar dentro de las claves de prioridad y vuelvo a decir una cosa muy importante

son muchos años es decir estamos poniendo esos fundamentos y en ese sentido hemos querido reforzar

yo creo que bienvenido sea porque de alguna manera por ahí va a discurrir el plan por líneas estratégicas y líneas generales pero también por detalles de salud que

adquieren una dimensión que muchas veces no se entiende antes nosotros no hemos distraído la atención a otras políticas que no sean las de salud y entendemos que hemos entendido nosotros bien lo que es trabajar sobre este plan muchas gracias